urteko hirugarren hiruhilabetekoak los datos de ambos indicadores son positivos y aun siendo prudentes permite mirar al futuro con esperanza

en euskadi la tasa de desempleo es del quince coma dos por ciento

respecto al segundo trimestre del dos mil catorce euskadi es donde los índices de paro son menos malos solo superada por nafarroa cuyo porcentaje de desempleo es del catorce coma nueve por ciento

muy lejos por el contrario de los índices de andalucía treinta y cinco coma dos canarias treinta y tres coma cuatro ceuta treinta y dos o comunidad valenciana con un veinticinco coma cinco por ciento por citar a algunos

muy preocupados y esperamos que las medidas adoptadas por el gobierno en el ámbito del empleo continúen dando sus frutos de forma que descienda hasta desaparecer el número de desempleados y desempleadas también se produjo en euskadi una bajada de la población desempleada del primer al segundo trimestre

al dieciséis coma quince por ciento por lo tanto los datos trimestrales del año dos mil catorce en su conjunto permiten mirar con cierto optimismo al futuro

queríamos saber si son reflejo de un nuevo escenario de creación de empleo en cambio las comunidades con peores datos de desempleo siguen desgraciadamente la senda contraria continúa incrementándose la tasa de desempleados y desempleadas

establecen la encuesta de población en relación con la actividad

señala que la tasa de paro de la comunidad autónoma de euskadi se sitúa en el catorce coma cinco por ciento cinco décimas porcentuales menos

son el sector primario la industria y la construcción

si tenemos en cuenta que han sido los sectores donde más duramente ha azotado la crisis beraz amaitzeko eta prudenteak izanda datu on

egoera larria izan las diferentes fuentes estadísticas coinciden en señalar datos positivos en relación a la evolución del empleo

con las habituales alteraciones de carácter estacional tanto la epa

y el propio paro registrado en lanbide siendo fuentes y medidas diferentes

estos datos están relacionados con la evolución de la actividad económica como siempre hemos dicho desde el gobierno vasco desde el conjunto de las administraciones públicas

ayudar a la creación de empleo pero que es la mejora general de esa actividad económica la que de verdad crea empleo de forma mayoritaria así constatamos que la aceleración del pib en el tercer trimestre de dos mil catorce ha sido

cuatro décimas más que el trimestre anterior esa aceleración del pib se ha traducido en un incremento del empleo

este dato refuerza el cambio de tendencia del trimestre anterior y supone el primer incremento interanual del empleo en casi seis años aunque con una cifra muy limitada

ese ritmo de creación de empleo es obviamente muy modesto e insuficiente para paliar los efectos de la larga recesión de los últimos años pero sirve para poner fin

que ha durado casi seis años ojalá ojalá sea definitivamente así nuestro registro de lanbide al cierre del último mes de septiembre arroja un

menos en el paro la semana que viene conoceremos los datos de octubre hay otros datos que son positivos y también esperanzadores si hablamos de contratos la comparativa interanual de los contratos firmados de enero a septiembre de dos mil catorce nos sitúa en un incremento

respecto al mismo período del año anterior y si observamos el detalle de los contratos indefinidos el incremento es del catorce coma treinta y seis por ciento no deja de ser otro indicador que refuerza ese cambio de tendencia del que hablamos en la reactivación económica

pero quisiera en este punto hacer una reflexión también sobre los contratos debemos de consolidar y fortalecer esa tendencia positiva para mejorar la calidad de los contratos la calidad del empleo

y muchos de ellos a tiempo parcial por eso es necesario aumentar esa tasa de contratación indefinida que sea capaz de promover de verdad proyectos e itinerarios vitales dicho esto y mirando a futuro en dos mil quince con una previsión de crecimiento del pib del uno coma siete estaremos

y de empezar a consolidar esa recuperación económica y del empleo esos datos positivos

y reforzar esas políticas que está desarrollando el gobierno eskerrik asko aburto jauna

la austeridad el control estricto del déficit y los recortes que de tal filosofía se derivan

no expansivos deprimen la economía aún más del control estricto del déficit y de la reducción de gasto no viene el crecimiento es justo al contrario

ha decidido con criterio acertado no cumplir

sobre el déficit público es acaso un irresponsable no todo lo contrario no quiere que la economía francesa empeore aún más señor montoro sea insumiso como valls guk ikusita

señor consejero usted viene aportando periódicamente a este parlamento datos sobre la gestión y el número de personas que reciben la renta de garantía de ingresos la prestación complementaria de vivienda

de información de forma periódica para saber si se están atendiendo adecuadamente

los socialistas no preguntamos por su origen por su lugar de nacimiento por su color de piel por su religión por su estado civil por su condición sexual o por

que reconoce ese derecho a personas en general y no a colectivos en particular en definitiva una ley que reconoce derechos

establecidos en los decretos que regula cada una de las prestaciones

la última respuesta que nos dio usted fue del catorce de octubre y versaba sobre el número total de personas perceptoras de la renta de garantía de ingresos dos mil ocho que se inició la crisis hasta la fecha y le pedíamos los datos por territorios preguntábamos por cuánta gente subsistía gracias a la renta de garantía de ingresos

menos que el mes anterior pero igual de dura de las cuales el veinticinco por ciento son personas que complementan sus pensiones

otro parlamentario de esta cámara le preguntaba por lo mismo que nosotros pero con un matiz a él solo le interesa saber dónde han nacido las personas

pasando necesidades que acudieron a lanbide demandando un empleo y ante la falta de trabajo y de ingresos en sus hogares para poder comer han tenido que recurrir a la renta de garantía de ingresos curiosamente es ahora cuando le ha entrado ese especial interés a este parlamentario y alcalde alavés

este mismo parlamentario se interesaba hace un año por las percepciones

nos queda claro que las únicas preguntas que ha formulado en dos años se refieren a la inmigración única y exclusivamente y llama la atención que no se interese por los que están trabajando

asociada a bajos niveles salariales y por la dificultad para la emancipación de los jóvenes

ezin du inork entzun no estamos oyendo nadie lo que está diciendo

fuera de españa y también nos queda claro que antes de hacer estas preguntas ya había acusado a todo un colectivo
por razón de nacionalidad a ver sarasua andrea a ver
no no siga no ez ez

le pregunta al consejero y no incluya al alcalde por favor

mi grupo me ha encomendado seguir este tema los datos referidos a esta respuesta me siguen resultando esclarecedores me explico quien primero acusa de no querer trabajo a los magrebíes después pregunta quiénes no quieren trabajar y ahora ya sabe que dieciséis

exactamente un cero coma veintisiete del total y también sabe que setenta y tres

un cero coma veintiocho tampoco aceptaron el trabajo que se les planteó además hemos sabido por un periodista del gara que se ha preocupado en buscar el dato que en este momento hay cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y uno ciudadanos extranjeros cotizando a la seguridad social en nuestra comunidad autónoma

con todos estos datos en la mano el parlamentario se va a presentar a su relación como alcalde mientras que se sarasua andrea

cuál es la pregunta por favor bueno le vamos a preguntar señor consejero que con todos los datos que usted nos ha aportado

y le ha aportado a este parlamentario y a otros le preguntamos si usted comparte con el grupo socialista

nahikoa da ella pregunta lo que quiere el consejero le va a contestar lo que quiere ya está aburto jauna zurea da hitza

sailburuok señora sarasua comparto su reflexión

sino si hay una posición predefinida un prejuicio y si por lo tanto se pregunta lo que se quiere preguntar para obtener el resultado ya predefinido el problema no está en las respuestas el problema está en las preguntas

así no se ha querido distinguir entre españoles y extranjeros

es decir se ha obviado a los nacionalizados qué pasa que

o incluso para que les voten por qué se elimina a los pensionistas por qué acaso se siente vergüenza de que si no fuera gracias a la

por un sistema de pensiones que las menosprecian no hay que engañar ningún pensionista cobra menos que quien percibe la rgi no hay que engañar por qué se dice por qué no se dice que los españoles

por qué no se dice cuánto aportan a la seguridad social sabiendo que en vitoria por ejemplo en álava

se dice se juega con lo emocional yo también voy a aportar algunos ejemplos qué le décimos señora sarasua a una persona marroquí que tras trabajar ocho años en la construcción se queda sin recursos

qué le décimos a una mujer que trabaja en un domicilio por quinientos euros o que cuida a personas mayores

qué les décimos a quienes la reforma laboral ha dejado en una situación de precariedad

que no ha contribuido fallecen sus padres y se queda sin recursos por qué no se dice que también los latinos que también a ellos se les quiere

o a quince como se me ha dicho a mi tantas veces en privado a quince por qué no por qué no se ha tenido el más mínimo interés en colaborar con lanbide para luchar contra el fraude

que se nos exija mejorar lo vamos a hacer lo vamos a intentar que se nos critique pero que se nos ayude también cuando aportamos los datos yo propuse le propuse

el ayuntamiento de gasteiz por ejemplo no ha firmado el protocolo con lanbide de colaboración con los servicios sociales se quiere confundir a la sociedad se quiere confundir y seguramente se le quiere manipular pero se utiliza una técnica irresponsable irresponsable y de falta absoluta de ética

solamente se quiere a aquellos inmigrantes que parece que pueden jugar bien a baloncesto

que paren ya yo creo que hay que exigir que paren ya que paren que no escupan al cielo

cuánto valen un puñado de votos conmigo que no jueguen a eso se los cedo de verdad se los cedo

no merecen la pena la política sin ética no es otra cosa que tiranía eskerrik asko aburto jauna

gracias señora presidenta bueno no sé si replicar a la señora sarasua o directamente al señor aburto porque no sé como va esto hoy señora presidenta desde luego quiero denunciar la utilización

del reglamento que se está haciendo hoy en esta cámara por parte de algunos parlamentarios y quizá sea debido después de haber constatado el ridículo que hicieron ayer

bide horretatik ez zaitez joan galdera egin edo bestela voy al asunto sí señor consejero a día de hoy

no tenemos noticias de la rpt de lanbide tres años

de aprobar la rpt de lanbide cuando la ley preveía un plazo de cuatro meses y ustedes también incapaces partido socialista de euskadi pnv incapaces de aprobar en tres años la rpt de lanbide isilduko zarete mesedez por eso le quiero preguntar señor consejero que valoración le merece este hecho después de constatada

la rpt de lanbide erantzuteko

mahaiburu andrea señora garrido la valoración que me merece es que es una enorme dificultad con la que cuenta lanbide para en este caso hacer una gestión mejor en la que estamos empeñados cada día nada más muchas gracias

que era lo urgente que era una necesidad que era lo que proporcionaba legitimidad al funcionamiento de lanbide en el cumplimiento de sus fines y objetivos

urgencia que mejor tener una rpt hoy que mañana y mañana que pasado que nos estamos jugando el futuro de lanbide a qué están esperando

a qué está esperando este gobierno para aprobar la rpt de lanbide un instrumento fundamental esencial y clave para el funcionamiento de lanbide y para el futuro de este organismo desde luego sin la rpt de lanbide lanbide carece del soporte básico para ejercer sus funciones

una nueva estructura organizativa sin rpt de lanbide el plan estratégico que usted hace pocos meses nos presentó en esta cámara a bombo y platillo

su responsabilidad señor consejero porque la rpt como usted nos ha dicho en esta cámara

de lanbide y una vez más en este caso con la no aprobación de la rpt de lanbide se está poniendo de manifiesto la absoluta ineficacia

de sus objetivos es que nos decía hace poco el señor consejero sin la rpt no vamos a hacer bien las cosas sin la rpt no estamos haciendo bien las cosas

y usted personalmente con la responsabilidad que tiene en el departamento que usted preside lo está haciendo fatal

que tanta demora tanta excusa barata además demuestra que quizá el retraso de lanbide

tenga que ver con otras cuestiones más bien de índole partidista y claro no sabemos ahora además también señor consejero si con el rechazo ayer de todos los grupos a la no aprobación de lanbide a la mayor brevedad posible cuestión que sí suscitó

y cuestión que sí suscitó también la aprobación y el apoyo del partido socialista

va a tener o va a considerar que tiene la cobertura suficiente para retrasar

señor consejero esta falta absoluta de resultados con la rpt de lanbide con la gestión de lanbide con la ineficacia de lanbide por su desastrosa

empleo y asuntos sociales es una cuestión clave y esencial para el futuro

bai mahaiburu andrea señora garrido penoso y ridículo el papel que está haciendo el partido popular

me alegro de que por fin hayan bajado a las cosas importantes a la gestión a la posibilidad de mejorar que por fin les preocupe eso y no otras cosas

vine a una comisión a presentar el plan con absoluta humildad a una comisión a darles a conocer el plan

para que su cumplimiento pueda ser exigido desde que me hice cargo del departamento en diciembre de ese año he manifestado en varias ocasiones en esta sede los graves problemas de gestión que nos genera en lanbide la ausencia de un rpt lo dije lo he dicho

y manifesté claramente mi compromiso de aprobarla cuanto antes y lo sigo manifestando el proceso lo asumió lanbide en colaboración con la dirección de función pública no es a mi departamento señora garrido a quien compete lo sabe usted perfectamente pero le interesa meterse conmigo

los trabajos de diseño de la rpt culminaron en junio de dos mil catorce si bien la viceconsejería de función pública ya había comenzado las negociaciones con la parte social

de negociaciones de negociar con la parte social de difíciles negociaciones ya

un proceso elaborado en el que la administración a petición de la parte sindical ha ido realizando sucesivos cambios hasta alcanzar definitivamente un total de novecientos dieciocho plazas en su propuesta final de rpt y eliminar aquella bolsa que tanta discusión generaba

y seguramente usted también la recordará y lo ha sido además por otras causas que voy a tratar de enumerar fusión de tres estructuras absolutamente

con poquísimos puntos de similitud en términos jurídico administrativos y estructurales que arrastran tres visiones diferentes con intereses diferentes unos acuerdos transitorios para la incorporación del sepe antiguo inem

un problema comparativo en términos salariales un rosario de sentencias judiciales negativas para las decisiones que en materia de personal se tomaron en los años dos mil once dos mil doce

de casi trescientos personas en régimen temporal bajo

y otras múltiples dificultades de naturaleza consustancial a la negociación creemos en resumen que lanbide necesita la rpt en el más breve espacio de tiempo lo seguimos diciendo en el más breve

en estos momentos estamos en un proceso previo de asignación provisional de puestos asignaciones que se están comunicando al personal y a pesar de eso señora garrido

que lanbide ha mejorado que lanbide sigue mejorando que lo hace día a día gracias al compromiso del personal de lanbide y al compromiso de este gobierno también señora garrido

upyd ha venido denunciando en solitario durante los últimos años la politización de las cajas de ahorros controladas durante largos años por partidos políticos sindicatos hace unos días estalló el escándalo de las tarjetas de crédito opacas utilizadas durante años por los consejeros de caja madrid hecho

de upyd hablamos de más de quince millónes de euros gastados por ochenta y dos consejeros y altos directivos de caja madrid y bankia en restaurantes viajes

ropa e incluso disposiciones en efectivo entre los años dos mil tres y dos mil doce todo ello al margen de los altos salarios las indemnizaciones millónarias y las pensiones fabulosas entre otras prebendas absolutamente injustificables y todo esto mientras se incrementaba el paro

durante los últimos cuatro años las retribuciones repartidas en el seno del comité de dirección ascendieron a setenta y uno millónes de euros de todos estos privilegios se beneficiaron responsables colocados a dedo por el partido popular el partido socialista izquierda unida y comisiones obreras especialmente llamativo es el caso del partido popular que mientras saquea las arcas públicas

ataca a los ciudadanos que viven aquí a los ciudadanos más indefensos a los ciudadanos que peor lo están pasando pretendiendo además quitarles las ayudas sociales

perplejidad e indignación entre los ciudadanos que además recuerdan perfectamente el dinero público que se destinó al rescate de determinadas entidades financieras la agencia tributaria investigará a los ochenta y dos directivos de caja madrid que hicieron uso de estas tarjetas opacas y según se ha dicho

si el uso de estas tarjetas se ha generalizado yo le pregunto

considera necesario que el gobierno vasco y las diputaciones forales investiguen la posible existencia de tarjetas opacas en las cajas de ahorro vascas

u otros posibles abusos o irregularidades que hayan podido existir está dispuesto el gobierno a liderar esta investigación para saber efectivamente si ha existido algún tipo de irregularidad

sí gracias señor consejero efectivamente ya sabemos lo que dice la actual ley y las normas establecidas pero queremos saber si en el pasado pudieron existir determinadas irregularidades en esas cajas

las cajas de ahorro vascas también han estado politizadas que ha sido lo que ha provocado en fin este desfalco de dinero público y por lo tanto como las de aquí también han estado politizadas

ha existido algún tipo de irregularidad esa es nuestra propuesta y lo que vamos a defender en el próximo pleno que se investigue efectivamente la gestión de estas cajas de ahorros

de irregularidades porque al fin y al cabo le preguntamos por qué piensa usted que los distintos partidos políticos durante largos años tenían tanto interés en estar dentro de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros

interés qué había detrás nosotros pensamos que hay que investigar todas las cajas de ahorros como consecuencia de la politización que han sufrido y por lo tanto las de aquí también usted ya no tiene tiempo para responderme seguiremos debatiendo en el próximo pleno ordinario del próximo jueves

gracias señora presidenta señorías señoras y señores consejeros

formular esta interpelación al consejero de empleo en relación con

reforma de la ley de cooperativas y esta no es una iniciativa de control sobre el calendario electoral no es lo relevante a nuestro juicio en este tema

cómo está la situación en un proceso de reforma legal de la regulación cooperativa la ley de cooperativas de euskadi de mil novecientos noventa y tres

lo relativo a la regulación de esta forma emblemática de economía social

un referente supuso un ejemplo jurídico que siguieron además otras comunidades autónomas donde la implantación cooperativa era relevante y era parte sustancial de su economía y de su empleo ahora parecía que tocaba la revisión de esta ley pero esta no llega

el paso del tiempo lo que afecta el tiempo a las cuestiones económicas empresariales las exigencias de la unión europea

a la administración a la organización del sector cooperativo las necesidades también en las empresas y en estas también de transparencia y de control interno en los procesos de decisión y otras cuestiones hacían entender

era necesaria y parecía que así también lo entendía y entendemos que de momento el gobierno también se mantiene en esas claves el gobierno también entiende que es necesario esa reforma de la ley bueno este parlamento ha tenido a lo largo de dos mil catorce dos importantes encuentros sobre economía social en unas jornadas auspiciadas por la universidad del país vasco y en colaboración

escuchar y oír a la propia universidad

de derecho de la economía social al observatorio vasco de economía social a expertos al propio sector

y ellos con las comisiones parlamentarias correspondientes y la propia dirección de economía social

hemos visto y hemos podido observar interesantes reflexiones y aportaciones en relación con

los criterios no son unánimes por lo que hemos podido ver pero ahí están seguro que se lo ha trasladado la señora

directora de economía social bien el gobierno vasco anunció en el acuerdo por el que se aprueba el calendario legislativo de la décimo legislatura dos mil doce dos mil dieciséis la elaboración

se expone en el mismo cuál es el objeto de la regulación yo me he referido a algunas cuestiones que son relevantes y que inciden pero el gobierno sí que detallaba que la razón básica del proyecto legislativo es la refundición

por razones de sistematicidad facilidad en la identificación y utilización de la

añadida de armonización para la interpretación coherente del cuerpo legal o de aclaración en otros casos se innovará en algunos aspectos referidos sobre

habla del cooperativismo de vivienda y habla de otros aspectos puntuales silencio administrativo en materia fiscal etcétera y ese etcétera también

que tienen que ver con cuestiones que vienen de fuera de la unión europea o con cuestiones que forman parte de las necesidades que determinados procesos han hecho patentes que hay que analizar digo procesos que

cooperativo y que se instalan seguramente en necesidades normativas

en consejo de gobierno y su remisión al parlamento vasco era el primer semestre de dos mil catorce cuestión que entendemos

nuestro objetivo es seguir profundizando en las necesidades de la apuesta por la economía social por el desarrollo del sector el cooperativo y los demás que componen esta fórmula económica y empresarial nosotros acabamos de recibir la comunicación requerida por el pleno de la cámara en marzo de dos mil trece y que podrá ser un buen marco

ya este parlamento ya se pronunció reconociendo la relevancia del movimiento cooperativista y de la economía social

recibimos la comunicación está y su debate pendiente para los próximos meses seguramente

para nosotros de relevancia nosotros

en pasos de consolidación y de fortalecimiento del conjunto de la economía social en euskadi sigue siendo una clave de futuro esas fórmulas no solamente la cooperativa

una clave de futuro hay que trabajar y en ese sentido sí que solicitamos que el gobierno nos aclare cuáles son los criterios cuáles son los propósitos del gobierno

y para la regulación y consolidación normativa del conjunto de la economía social en euskadi eso pasa creemos sigue pasando salvo que usted nos diga lo contrario por esa revisión por esa reforma por esa nueva

vuelvo a decir lo relevante no es el incumplimiento del calendario legislativo eso está ahí eso es innegable sino que se haga una buena ley pero pronto
muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

sailburuok legebiltzarkideok señor barrio agradezco sinceramente su ofrecimiento de trabajar en conjunto

nuestro sistema cooperativo la responsabilidad en este caso señor barrio evidentemente no es del partido popular es del gobierno que ha sido quien no ha presentado la ley en el momento en el que

y voy a tratar de explicar las razones creo que fundadas para esa cuestión antes de nada como usted ya ha aclarado en su intervención inicial

en consejo de gobierno y remitida posteriormente a esta cámara quizá lo podríamos haber hecho antes también pero como usted sabe

ha retrasado de alguna manera la situación el documento reconoce la relevancia de la economía social vasca y describe también su situación en un periodo

por lo que los datos no reflejan en este caso la incidencia que tendrá la caída de la cooperativa de trabajo asociado más emblemática seguramente y con más socios

seguir analizando la situación con relación a la ley de cooperativas

la declaración concursal de insolvencia a fines de dos mil trece de la cooperativa de trabajo asociado más característica y con más socios y socias

fundamentalmente respecto a una cuestión de relevancia me refiero a la responsabilidad de los socios y socias incluso tuvimos que hacer un informe en aquel momento

esta situación nos obligó también a nosotros a una reflexión más profunda sobre otros aspectos legales que no se habían previsto inicialmente pues creemos que afecta a elementos básicos de regulación cooperativa

indiscutidos aspectos que se cuestionan por su concurrencia con la ley concursal así mismo el once de abril de dos mil catorce la dirección de economía social recibió una carta de la confederación de cooperativas de euskadi de konfecoop una carta

la ampliación de los plazos previstos para contar con el tiempo necesario para realizar nuevos procesos de reflexión dentro del movimiento cooperativo también en este caso

en profundidad creemos por lo tanto que un mínimo criterio de prudencia aconsejaba ampliar el calendario inicialmente previsto para examinar nuevas soluciones

en la normativa cooperativa vasca no obstante este gobierno yo le traslado ese compromiso de presentar un proyecto de ley de cooperativas el año que viene con respecto a los criterios y los propósitos de los cambios normativos para la futura ley de cooperativas debemos señalar que la razón básica del proyecto legislativo

la refundición de los diversos textos legales que han ido modificando a lo largo del tiempo la ley cuatro barra mil novecientos noventa y tres

y también de utilización de la normativa en vigor también por razones de seguridad jurídica resultaba razonable la elaboración de un texto único en el que se incluyeran debidamente armonizadas todas las disposiciones aplicables a las cooperativas a las que se les aplicaba esa ley cuatro barra mil novecientos noventa y tres de veinticuatro de junio por texto

esto es unir en partes conformar un texto único con las modificaciones que se han ido adoptando sustituyendo por lo tanto los textos originales por los textos modificados sin embargo pronto se advirtió que convenía además revisar ciertos extremos que durante toda la vigencia de la norma no fueron modificados o desarrollados su adecuación a la realidad actual en unos casos

los aspectos que estimaban conveniente revisar en su caso y en su caso modificar son los siguientes infracciones y sanciones como usted ha dicho en concreto respecto al papel que desempeña la administración en sus funciones inspectora y sancionadora

a día de hoy el cooperativismo de vivienda tal y como usted también ha señalado

la importante conflictividad suscitada en este ámbito exigía revisar

intensificando la participación desde un principio de los socios usuarios en tercer lugar el consejo superior de cooperativas en el mismo sentido y en cuanto a organismo público la refundición explicitada es una oportunidad para repensar aspectos funcionales y organizativos

superior de cooperativas y aspectos jurídicos técnicos que eran susceptibles de mejora en un análisis de técnica jurídica y como siempre ocurre

también de la aplicación de la norma legal cooperativa fundamentalmente en el ámbito registral se han advertido diversos extremos que son susceptibles de mejora

delicados la extinción o transformación de cooperativas puede ser también el momento adecuado para considerar nuevas regulaciones respecto

la reciente y muy importante problemática derivada de la insolvencia que afecta también a las cooperativas es evidente la necesidad de clarificar temas como la responsabilidad de los socios y socias

lo referente a los instrumentos financieros existentes al servicio del sector cooperativo con la modificación de la ley se pretende facilitar el escenario y en todo caso los criterios

del movimiento cooperativo vasco finalmente ya que hablamos de la regulación y consolidación normativa del conjunto de la economía social en euskadi quiero recordar que la ley cinco barra dos mil once

a nivel estatal un marco jurídico que integra cooperativas mutualidades fundaciones asociaciones que lleven a cabo actividad económica sociedades laborales

y entidades singulares euskadi tiene título competencial por la forma jurídica sobre algunas de ellas pero no sobre otras por ejemplo los centros especiales de empleo

la competencia de ejecución de la regulación estatal por estructura entran dentro de la dirección de economía social las cooperativas las sociedades laborales y las empresas de inserción pero no las mutualidades que estarían dentro del ámbito del departamento de hacienda y finanzas

o las cofradías de pescadores y sociedades agrarias de transformación que están en el ámbito del departamento de desarrollo económico y competitividad entendemos así mismo

no impide la promoción ni la difusión de la economía social

para proporcionar coherencia a las acciones que se tomen respecto a las entidades que componen la economía social en su conjunto

y brevemente bueno es una cuestión relevante

se ha visto y como se ha reconocido desde luego hay materia para trabajar desde luego desde esa apelación y esas reflexiones sobre la responsabilidad de los socios y socias de las empresas cooperativas hasta los aspectos

pasan por la inspección o tasación o los aspectos puramente de gestión y de organización

esta cuestión y seguramente está claro en el retraso de lo que era un compromiso

ya pudimos ver nosotros también que el sector también pues teníaalgunas dudas el compromiso del gobierno es que este año no ha podido ser

nosotros trataremos también de ayudar al gobierno para que eso sea así

para fijar algunos criterios que hoy han salido a mí me preocupa señor aburto una cuestión que no sé como la valorará usted que es la frialdad que

entre el sector y esta confecoop pero hay otras asociaciones que aglutinan intereses cooperativos y el gobierno vasco nos da una sensación de frialdad o de distancia

la oposición del presidente o del representante de confecoop en

la reforma de la ley en esa jornada parlamentaria a la que me refería yo con anterioridad

no vemos una explicación no sé forma parte eso de las desconfianzas que se ha creado con asuntos como el de la situación de fagor o el de otros temas las aportaciones subordinadas u otros asuntos de la gestión

desconfianza o vemos determinado grado de frialdad

en ese sentido y viendo que hay materia para trabajar que es una cuestión de relevancia que hay que hablar de muchas cosas dentro de la legislación que afecta a las cooperativas

en el país vasco y de la que depende de su departamento

ver un poco si hay relaciones con el sector con ese distanciamiento que vimos aquí o que se produjo en esa carta

vimos que habría que no supimos entender muy bien

en el sector en relación con la reforma o con un proceso de reforma de la ley cooperativa

si el gobierno hace lo suficiente para convencer al sector de que esa reforma

no solamente hay que arreglar cuestiones sino que hay que demostrar que la capacidad normativa

acompaña también a la capacidad de generación de empleo y la capacidad de crecimiento económico que en teoría

pues está siendo superada también de cara a esa reforma muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko

sí gracias señor barrio por el tono por sus reflexiones por sus aportaciones

que acepto gustoso para trabajar en conjunto para impulsar el desarrollo de esta ley coincido en que es relevante

es de calado y hay dos cuestiones que son de una enorme complejidad en estos momentos y que son seguramente complejas

por ser deudoras de lo ocurrido en el caso de fagor me estoy refiriendo a la responsabilidad de los socios y socias así responden con sus aportaciones o si responden con el conjunto de su patrimonio es una cuestión de enorme delicadeza que afecta de lleno a la vida de cada una de las personas socias y también de otro elemento que ha sido consustancial al movimiento cooperativo

específicos especiales de financiación y lo que ha ocurrido con ellos en los últimos tiempos de los cuales esta cámara ha sido

por lo tanto hay que trabajar esas dos cuestiones con consenso con cuidado con

del ámbito cooperativo de la comunidad científica de todos y así lo pretendemos hacer el por qué de la carta

yo creo que si se ha producido esa percepción

por lo menos en lo que se refiere al gobierno todo lo contrario tenemos firmados en estos momentos dos protocolos de colaboración uno con confecoop

que están funcionando que han sido agradecidos

por ambos sectores estamos intentando impulsar la participación del movimiento cooperativo

incluso vamos a proponer en la próxima mesa tripartita

la presencia además de confebask del propio movimiento cooperativo y sabemos que esto es complicado que esto es difícil porque sabemos que vamos a encontrar la oposición seguramente de las patronales vascas pero creemos que hay que darle esa relevancia al movimiento cooperativo y por lo tanto nada más lejos

en nuestro modo de ver que la frialdad pero por qué se produce la carta yo entiendo que

la seña de identidad seguramente del movimiento cooperativo por ser el grupo más importante en estos momentos todavía se encuentra sin presidencia se encuentra

de haber realizado esa asamblea esa reflexión estratégica en el que tiene que definir

y nosotros en ese momento y en esa reflexión metemos la cuña de la ley de cooperativas ni más ni menos que de la ley que va a regular ese sector entendemos que esto es una confluencia difícil

le gustaría que esa demora fuera aún mayor sin embargo nosotros creemos que el compromiso que el gobierno tiene con esta cámara y con el propio sector en su conjunto hace que

texto cuyo borrador tenemos ya en estos momentos hemos trabajado con las tres universidades con mondragón con deusto y con la universidad del país vasco

y que confiamos que tal y como he manifestado el año que viene sin ninguna duda ese texto entrará en la cámara nos gustaría que para ese momento

hubiera procedido ya al nombramiento de sus órganos ejecutivos hubiera procedido a esa asamblea y reflexiones

de un texto de tanto calado tan especial y que tanta influencia va a tener en ese sector cooperativo que todos y todas queremos cuidar y preservar

estamos en un contexto de recuperación económica moderada aunque sujeto a riesgo sobre todo por lo que está ocurriendo en alemania en francia y en italia

la estimación de todo el año sigue estando en el uno por ciento y del uno coma siete de crecimiento en el dos mil quince crecimiento empujado por la demanda externa e interna

hace dos años estábamos en números negativos por eso los datos desde ese punto de vista son de alguna manera esperanzadores con respecto al empleo tanto el paro registrado en lanbide como lo últimos datos de la encuesta

han arrojado también resultados más positivos en este tercer trimestre en todos los indicadores y en los tres territorios estamos de media

cuando se sustancie el pleno monográfico que vamos a tener el próximo viernes siete de noviembre podremos profundizar más en los datos pero le puedo avanzar que en los últimos dos años

el riesgo sobre los colectivos más vulnerables pero que en términos generales

un papel crucial en el mantenimiento de las condiciones de vida de miles y miles de familias vascas por eso es más urgente que nunca recuperar el consenso que esta cámara siempre ha tenido a ese respecto

están llegando con una mayor intensidad y eficacia precisamente a esos colectivos

en la presentación del proyecto de presupuestos para este año uno de los objetivos estratégicos en el orden socioeconómico es el de garantizar las coberturas de las necesidades básicas de las personas preservando nuestro modelo de bienestar

de hecho es el departamento de empleo y políticas sociales el que presenta comparativamente un crecimiento con respecto al año anterior más importante ello obedece fundamentalmente a la dotación de la rgi y la pcv

aunque de esto tendremos ocasión de hablar en el debate presupuestario

y aunque no es competencia de este departamento las políticas públicas para hacer frente a la crisis incluyen también en el esfuerzo inversor que en conjuntos se realiza en los capítulos sexto séptimo y octavo que se incrementan en un tres coma uno por ciento

a mil doscientos veintitrés para el año que viene en segundo lugar el programa marco

que incluye los planes que se gestionan desde el departamento y desde lanbide

le puedo recordar como referencia la evaluación de las actuaciones de dos mil trece datos que ya expusimos en su día en comisión durante el año dos mil trece con una inversión pública de doscientos cuarenta y cinco millónes de euros y una movilización de recursos privados por valor de cuatrocientos ochenta y siete millónes

se ayudó a mantener cuarenta y seis mil puestos de trabajo y se formó a ciento siete mil personas no es suficiente

pero podemos preguntarnos también por el coste que supondría no haber tenido ese plan este año

además de los planes locales y comarcales de empleo de los que participan en colaboración la mayoría de los ayuntamientos mancomunidades y cuadrillas de euskadi y en tercer lugar la renta de garantía de ingresos la prestación complementaria de vivienda las ayudas de emergencia social y los programas de alquiler de vivienda social

como ya lo ha hecho porque son cruciales en el mantenimiento de la cohesión social el mantenimiento de unas condiciones de vida suficientes para miles y miles de familias

y como ciudadanos y ciudadanas de euskadi seguramente me dirá que la cuantía de la rgi debería ser mayor que debería también llegar a más personas que la partida de las aes hay que subirla más y que pongamos más viviendas

a mí también me gustaría comparto muchas de las cosas que acabo de decir y que seguramente usted también diría pero para todo no llega lo sabemos nosotros lo sabe bildu en gipuzkoa el pp en araba

por eso creo que es importante no perder la referencia de que hay que hacer más

seguir avanzando pero poner en valor lo que tenemos y preguntarnos siempre por cuál sería el coste que supondría para el conjunto de esta sociedad y sobre todo para aquellas personas más vulnerables socialmente hablando

eliminar esas partidas eliminar esas políticas que aunque insuficientes aportan dignidad a miles y miles de familias para otros que nos contemplan desde fuera

somos el modelo a seguir nos admiran por el sistema se quedan pasmados por el sistema por imperfecto que este sea

que todavía muchas familias viven incluso a pesar del sistema y mientras nosotros empeñados en armar

detrás de la cual si no somos capaces de pararla vendrá una tormenta eskerrik asko aburto jauna arrondo andrea zurea da hitza

porque creo o sigo creyendo que es muy importante criticar para avanzar pero desde la puesta en valor de los pasos dados y de la situación que vivimos en nuestro entorno una de las consecuencias mayores de la crisis ha sido la caída dramática del empleo y además ha afectado a la parte más débil menos estable y también a la menos cualificada más del setenta y cinco por ciento de las personas que hoy sufren situaciones reales de pobreza se vinculan a parejas con hijos e hijas y a familias monoparentales

ha perdido un trece coma cuatro por ciento de sus ingresos

si nos situamos entre el diez y el veinte por ciento de la población más pobre

sería del ocho coma dos por ciento no sorprenderá que señale que a la vista de estos datos podríamos afirmar que hay

y que hay una situación de desigualdad pero lo es mucho menos de lo que sería si nuestra sociedad no hubiese apostado por mantener su sistema de garantía de ingresos seguimos contando con un modelo social competitivo en europa

en lugar de haber perdido el trece coma cuatro por ciento hubiera perdido el veinticinco coma siete por ciento

entre el treinta por ciento más desfavorecido de euskadi son datos de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales

que daremos en los próximos días y que tendremos ocasión de debatir en el pleno monográfico

en españa en dos mil trece la proporción es del tres por ciento en euskadi en términos del umbral español

la proporción es del seis coma dos en euskadi frente al cuarenta y dos coma uno por ciento

la proporción es del veintidós coma cinco en euskadi pero euskadi no solo

con españa sino también con algunos países punteros en europa cinco coma dos por ciento de preparación material severa pero cinco coma cuatro en alemania por ciento de personas con dificultades para hacer una comida proteínica cada dos días ocho coma cuatro en alemania es verdad

en situación de necesidad tanto españolas como extranjeras pero han sido atraídos por la percepción de que en euskadi se funciona de manera diferente aún nos podemos ver como una tierra de oportunidad y ese futuro de oportunidades al que ha contribuido nuestro sistema de protección social es aquello a lo que no estamos dispuestos

la respuesta es muy sencilla si piensa el gobierno vasco cumplir el mandato parlamentario aprobado en esta cámara hace ocho días en relación a mantenimiento de las ayudas de emergencia social a su fortalecimiento lo cierto es que el jueves

dos cosas por un lado se instaba al gobierno a ampliar la dotación presupuestaria destinada a financiar las ayudas de emergencia social para este ejercicio dos mil catorce y por otro lado se instaba al gobierno vasco a que en el proyecto de presupuestos

para atender las solicitudes de las ayudas de emergencia social que cumplan con los requisitos establecidos para tal fin queríamos saber si es voluntad de este gobierno cumplir

señor maneiro este gobierno siempre tiene la voluntad de cumplir los mandatos parlamentarios y lo digo con conocimiento de causa sabiendo lo que estoy diciendo voy a seguir siendo un pesado de aquí

para intentar conseguir que seamos capaces de ampliar

soy consciente de la enorme dificultad que tenemos entre manos soy consciente de que tenemos que preservar lo básico de que tenemos que

para que llegue a todas las personas que la necesitan y porque además es un derecho subjetivo

de que el presupuesto del año que viene también va a ser un presupuesto complicado somos conscientes y hemos incrementado humildemente la cantidad de manera pequeña

presidenta pues bien señor consejero si este gobierno tiene voluntad política para dar cumplimiento al mandato parlamentario lo tiene todo ya porque

de voluntad política es decir si este gobierno tiene voluntad política de cumplir este mandato lo cumplirá en todo caso nosotros se lo exigimos porque ya digo y se lo suelo repetir a menudo dinero ya hay y es cuestión de señalar bien las prioridades

aportaran sin ir más lejos ciento cincuenta millónes de euros a la construcción de san mamés hubo voluntad política para ello hubo también voluntad política para aportar

hay voluntad política por parte de este gobierno para aportar nada más y nada menos que diez millónes de euros para las obras de un campo de fútbol en san sebastián anoeta ha habido voluntad política para ello hay también voluntad política por parte de este gobierno para incrementar las partidas destinadas a la euskaldunización

a e i te be es decir es cuestión de voluntad política

marque bien las prioridades y este asunto de las ayudas de emergencia social es un asunto prioritario mucho más prioritario que todos los asuntos que le acabo de señalar

exactamente a las personas que peor lo están pasando que más necesidades tienen por lo tanto es una cuestión de voluntad política y de marcar bien las prioridades

con voluntad política por lo tanto priorizando correctamente

el gobierno vasco podría perfectamente si quisiera cumplir el mandato parlamentario en relación a la mala gestión podemos recordar aquí los casos epsilon e hiriko que han costado a las arcas públicas nada más y nada menos que sesenta y cuatro millónes de euros o los treinta millónes de euros que tenemos que pagar los ciudadanos vascos como consecuencia de la multa impuesta por las vacaciones fiscales en fin por no hablar de la reforma del entramado institucional

o un mayor empuje para luchar más y mejor contra el fraude fiscal haciendo todo esto con voluntad política por lo tanto para hacer todo esto y para priorizar bien perfectamente se puede cumplir ese mandato parlamentario para incrementar las ayudas de emergencia social en la cuantía suficiente para el próximo ejercicio y también para este por lo tanto con voluntad política espero que pueda hacerse nosotros insistiremos de aquí

señor maneiro parece que con eso está todo hecho le miro al señor gatzagaetxebarria para ver si ese mantra nos puede de alguna manera

que la voluntad política no es suficiente sabe que hay que analizar la realidad y ver dónde estamos

qué pasos podemos dar para preservar lo que tenemos y avanzar tenga cuidado señor maneiro

sé que sus posibilidades de responsabilidad de gobierno seguramente las ve muy lejanas pero

como al señor pablo iglesias que desde podemos

que el referente en materia de política social es esta comunidad por eso digo que desde fuera nos analizan casi siempre

o alguien de su partido tenga responsabilidades de gobierno en algún territorio también diga que lo que pasa en euskadi debe ser el modelo a implantar por eso preservemos lo que tenemos analicemos la situación y veamos hasta dónde podamos llegar siempre sí siempre cumpliendo con los derechos subjetivos

de los que este país se ha dotado en esta cámara la renta de garantía de ingresos la prestación complementaria de vivienda y también las ayudas por hijos e hijas

hasta donde podamos intentando avanzar intentando mejorar cada año poniendo más dinero a pesar de las dificultades presupuestarias el año que viene van a existir sabe usted mejor que yo o también como yo que en materia de protección social en materia de servicios sociales

nunca van a ser suficientes para atender a las necesidades tenemos que ser capaces de buscar el equilibrio adecuado y de llegar a la gente que más vulnerable está a la gente que peor lo pasa

que nuestras posibilidades de actuación son limitadas señor maneiro

aburto dice usted que este gobierno siempre tiene la voluntad de cumplir con el mandato parlamentario y que va usted a seguir insistiendo en ampliar la partida destinada a las aes

el mandato parlamentario va más allá le pide la máxima prioridad porque es una necesidad para ahora

habla usted del mantra de la voluntad política se lo acaba de trasladar

es evidente y lo digo señor consejero porque en este momento estará usted de acuerdo que tenemos casi ochenta mil vascos y vascas que no cobran ni prestación por desempleo ni subsidio un dato que desde luego es alarmante

de prestación del estado y claro dependen de las prestaciones sociales vascas el diecisiete por ciento de los hogares vascos llegan a fin de mes con dificultades y con mucha dificultad y la crisis ha multiplicado el número de las familias vascas sin recursos suficientes para atender sus gastos habituales y muchas de ellas viven de sus pobres salarios

es evidente que con lo presupuestado este año no llega ustedes lo han reconocido y su gobierno debe atender esa necesidad señor consejero si quiere lo pueden hacer tienen el respaldo y el mandato reiterado de la mayoría de este parlamento el pasado año in extremis

fue insuficiente y tardío pero fue un alivio este año esa cuantía se ha incorporado a los presupuestos

el gobierno lo sabe desde junio cuando los ayuntamientos vascos empezaron a lanzar las primeras llamadas de socorro llamadas que se intensificaron en agosto y en septiembre

que el año anterior y de nuevo ellos quienes intentan apurar cantidades con sus propios

estas ayudas de emergencia social para las personas y las familias pero no llegan es imprescindible que el departamento de empleo y políticas sociales

a las graves consecuencias que la crisis económica está causando en las familias vascas por eso vuelvo a insistir

las ayudas de emergencia social para este año como lo ha pedido este parlamento hace ocho días

no voy a insistir en lo anterior señora sarasua lo que si voy es a comentar dos cuestiones que figuran en la justificación de su pregunta

calculan que para atender absolutamente todas las demandas que prevén recibir necesitarían diez millónes más

que pondrán todo o parte de sus propios presupuestos lo que es sin duda encomiable y hay otros que al igual que nos pasa a nosotros

tendrán dificultades no tendrán más recursos para disponer la segunda creo que llegar al cien por ciento de las solicitudes es casi casi tiende a lo imposible estoy convencido de que si pudiéramos ampliar en diez millónes más la partida el año que viene

estaríamos en la misma situación y estaríamos en la misma situación porque y esto es lo que ocurre con muchas de las prestaciones sociales la

genera mayores y nuevas demandas y en definitiva como le he dicho antes nunca los recursos van a ser suficientes para atender a las necesidades los requisitos para acceder a las aes son amplios

prever son los servicios sociales de base los que han de ponderar esas situaciones y esto nos lleva a la tercera cuestión

no solamente emplaza a poner cuantías suficientes al gobierno vasco que también lo hace pero también obliga obliga a los ayuntamientos a gestionar adecuadamente el recurso disponible haciendo si fuera necesario y lo dice con carácter imperativo como usted sabe señora sarasua haciendo minoraciones si fuera necesario como hacen algunos ayuntamientos

vemos que también las prácticas las realidades son dispares eskerrik asko aburto jauna sarasua andrea zurea da hitza

y los recursos se buscan ustedes se lo hemos repetido varias veces en esta tribuna los encontraron para pagar la multa de las vacaciones fiscales nos bastaría la mitad de esa cantidad y el doble de rapidez para atender lo que nos piden desde todos los ayuntamientos

si les hace falta ofrezco el apoyo de mi grupo para que ustedes traigan una ley urgente de lectura única y en tres semanas cambiamos esas partidas sobrantes este año y evitamos que no se vayan al cajón de remanentes si lo ponemos al servicio de los ciudadanos que lo necesitan hoy

y les hacemos esta propuesta si fuera necesario si siguen viendo obstáculos

me refiero que la voluntad en caso de necesidad no sirven decía el lehendakari urkullu que lo escuché yo

y le pido señor consejero que arriesguen y que lo acompañen con hechos ampliando

de agua insisto señora sarasua el pasado

lo pudimos hacer y ampliamos la partida conseguimos dos millónes y

se nos dijo entonces que el incremento no era suficiente para dar respuesta y les recordé en aquel momento

las cantidades presupuestadas por grandes que sean y crezcan año tras año nunca son suficientes

nunca nunca se ha destinado tanto dinero a esta materia le recuerdo que la prestación complementaria de vivienda hace muy poquitos años

estamos en más de cien millónes de euros nunca nunca tanto dinero y todavía a día de hoy a pesar de haber realizado esa modificación legislativa

se destinan a materia de vivienda ojalá que la situación nos hubiera permitido actuar de manera similar

decir hoy y a mí más que a nadie seguramente que

con esa proposición no de ley de este parlamento y que hemos sido capaces a mí seguramente tanto como a usted señora sarasua pero algo ha cambiado hoy nos ofrecen una ley una ley de lectura única qué pasó en el año dos mil once

no se estableció la prestación de ayudas de emergencia social como

sí gracias presidenta señor consejero consecuencia fiscal firmado hace aproximadamente un año la mayoría de los impuestos en euskadi han quedado armonizados solo ha quedado fuera de esta circunstancia uno el impuesto de patrimonio denominado en gipuzkoa impuesto sobre la riqueza

ha quedado desarmonizado el impuesto que los expertos más aconsejan que esté armonizado para evitar deslocalizaciones y fugas

remediarlo los tres territorios vascos mantendrían vigentes sus respectivos impuestos dejando el impuesto de patrimonio como el gran tributo pendiente de armonizar

aprobada hace un año y que supuso la equiparación del irpf del impuesto de sociedades y del impuesto de sucesiones y donaciones los expertos en

para evitar deslocalizaciones y fuga de capitales ese es el impuesto de patrimonio fundamentalmente por una razón la facilidad que tienen las grandes fortunas para cambiar su domicilio lo cierto es que el partido nacionalista vasco el partido socialista de euskadi y también el partido popular se comprometieron no hace demasiado tiempo hace unos meses este mismo año

sin embargo lo cierto es que no se ha dado ningún paso nosotros pensamos que la armonización es necesaria y aconsejable y debe llevarse a cabo cuanto antes a día de hoy hay dos modelos muy diferenciados por un lado el de gipuzkoa

y el de bizkaia y álava aprobado por el partido nacionalista vasco y el partido

las diferencias entre unos y otros los conocemos bien y creo que no merece la pena que aquí las expliquemos porque ni siquiera es esto lo importante

o en qué podrían mejorar cada uno de estos dos modelos lo importante para nosotros es reclamar la armonización fiscal que durante los últimos tiempos ya digo todos los partidos políticos creo que sin excepción y los expertos en fiscalidad han venido reclamando

partido nacionalista vasco insistía hace unos meses en esta necesidad de armonizar y se decía expresamente y literalmente que para evitar males mayores ya digo independientemente del contenido de cada uno de los impuestos hoy día en vigor de esos dos modelos lo fundamental

es que haya un solo modelo y que la armonización fiscal por lo tanto sea plena en euskadi el veintitrés de enero de este mismo año

y cerrar el círculo el ebb ya estudia el asunto a los partidos para cerrar un acuerdo cuanto antes en fin esto es lo que nosotros queremos que cuanto antes de un modo haya un acuerdo que haga posible la armonización del impuesto de patrimonio para cerrar efectivamente ese círculo la pregunta por lo tanto

qué pasos pueden darse a partir de ahora y en concreto y por lo que respecta al gobierno vasco qué actuaciones piensa llevar a cabo este gobierno para armonizar
el impuesto de patrimonio gracias eskerrik asko maneiro jauna

la filosofía que utiliza y las vueltas que da a las cosas

le hemos preguntado algo muy concreto y es exactamente qué es lo qué va a hacer el gobierno para

un relato histórico que en fin más o menos conocemos nos ha explicado efectivamente el contexto geográfico en el que nos movemos podemos compartir la necesidad de armonizar el impuesto sobre el patrimonio en euskadi a día de hoy usted comparte con nosotros y piensa que sería posible hacerlo cuanto antes esto como primera pregunta clara si existe esa necesidad de armonizar el impuesto sobre el patrimonio y si existe una mayoría incluso parlamentaria una mayoría de grupos parlamentarios que abogarían esa decisión de dar los pasos necesarios para armonizar el impuesto sobre el patrimonio si estamos de acuerdo en el objetivo se trata de decidir

ese objetivo que ya digo todos los expertos en fiscalidad lo consideran absolutamente imprescindible falta como en tantas otras cosas

política y creo que falta decidir exactamente qué instrumentos utilizamos para lograr ese objetivo creo que hay que hacerlo cuanto antes

a través de los acuerdos en las distintas juntas generales de los territorios históricos a través de la utilización

aunque es cierto que esta ley parece ser que deja fuera este impuesto de patrimonio otros señalan que efectivamente esta ley podría utilizarse para ello o cómo lo hacemos a través de un acuerdo en el órgano de coordinación tributaria o otra posibilidad que este parlamento

sobre fiscalidad y haya una mayoría de grupos que se pongan de acuerdo para decidir cuál es el impuesto de patrimonio vigente en cada uno de los territorios históricos estas yo creo que son las opciones que tenemos entre manos y que habrá que decidir nosotros vamos a proponer una para de un modo u otro conseguir ese objetivo que creo que todos compartimos independientemente de cuál sea el contenido definitivo

es que el impuesto de patrimonio sea el mismo en el conjunto de euskadi en cada uno de los territorios históricos por lo tanto bien a través de los acuerdos

juntas generales de los territorios históricos bien a través de la ley de harmonización fiscal

o bien vía parlamentaria a través de este parlamento tenemos que ser capaces de lograr ese objetivo que creo que todos compartimos yo le pregunto cuál considera usted que es el paso aconsejable que debería darse cuál es el instrumento adecuado para lograr ese objetivo por qué abogaría usted
en concreto porque usted también es un experto en materia fiscal señor consejero eskerrik asko maneiro jauna

vamos a hablar un poco de cultura y del nuevo plan de cultura

el proyecto kultura auzolanean dos mil catorce dos mil quince como todos conocemos o como podemos conocer

como un instrumento para acordar entre agentes públicos y privados la visión estratégica los criterios de actuación las prioridades para el conjunto de la cultura vasca

interinstitucionalmente consensuada entre las administraciones vascas en materia cultural para dos mil catorce dos mil quince

exitosas las últimas planificaciones en materia de cultura no han sido

desde el gobierno vasco en anteriores experiencias y no lo han sido y se lo aseguro que no lo han sido

tampoco el contrato ciudadano por las culturas dos mil once dos mil doce

desde luego esos fines de implantación de arraigo cultural para los que tenían que estar concebidos

está claro que ante los importantes recortes que ha habido en materia de promoción de la cultura y del patrimonio histórico artístico en los últimos presupuestos

en apostar por ideas decididas o abiertas para el desarrollo de una política cultural

sin dirigismos ni de politizaciones eso está claro y eso yo creo que debe ser una hoja de ruta también una guía

los proyectos culturales en ese sentido son los planteamientos que queremos hacer ya hemos visto como

el proyecto de kultura auzolanean pues actualmente en marcha pues ha tenido unas etapas faltan algunas su arranque en julio de dos mil trece el documento

el sector y las aportaciones en marzo abril dos mil catorce las incorporaciones de las aportaciones de las propuestas

la reciente comisión interinstitucional de nuevo y bueno la valoración de esos proyectos que

los dos bloques de proyectos por decirlo así y

buen momento después de ese arranque y después de esa andadura de conocer el trabajo y de que podamos verlo

con técnicos trabajando en los respectivos proyectos también la comisión interinstitucional ya hemos visto también antes que el consejo de la cultura también supervisó

otros diez para el dos mil quince pues algunos también previsiblemente en marcha

del estado de los proyectos veinte proyectos

políticas fiscales ámbito de la cultura análisis de financiación proyecto kulturklik hábitos y consumo

la promoción de la cultura con una serie de cuestiones que afectan a la danza a la digitalización de

al teatro a las nuevas tecnologías al cine y los proyectos de patrimonio cultural en relación

museos o patrimonio cultural o digitalización de bibliotecas o lectura pública y esos dos bloques

a caballo entre el dos mil catorce y el segundo bloque proyectos a abordar en dos mil catorce y según dice con resultados previstos en dos mil quince pero el primer bloque proyectos a abordar en dos mil catorce y con resultados

el gobierno que la señora consejera nos informe efectivamente

para conocer la marcha los resultados el camino de esas comisiones técnicas de esas comisiones interinstitucionales de saber y en ese sentido

kultura auzolanean con la puesta en marcha de esos proyectos qué resultados está teniendo

el documento inicial que recoge la planificación estratégica de dichos proyectos para los años dos mil catorce y dos mil quince

posteriormente estuvo a disposición del sector y de la ciudadanía en general a través de la página web para recibir aportaciones en total se han recogido cuarenta y nueve aportaciones

dichas aportaciones fueron presentadas en la reunión de la comisión interinstitucional de la cultura celebrada el veintinueve de mayo de dos mil catorce e integradas al plan

y finalmente se llevó acabo la presentación y contraste del plan kultura auzolanean dos mil catorce dos mil quince ante el renovado consejo vasco de la cultura en la sesión plenaria

en dicha reunión el propio lehendakari presentó kultura auzolanean como el instrumento

en colaboración con el resto de instituciones diputaciones forales

para planificar el marco de intervención estratégico en el ámbito de la cultura para los próximos dos años tal y como he mencionado con anterioridad ello se hace primando el trabajo compartido y efectivo tanto en el sentido de favorecer la participación de los

como en el de trabajar en proyectos de carácter concreto de hecho se ha realizado un gran esfuerzo previo de concreción para elaborar una lista de veinte proyectos prioritarios esto no significa que los veinte temas planteados en kultura auzolanean sean los únicos en los que se va a trabajar pero sí son los temas que de algún modo se han definido y priorizado desde la perspectiva interinstitucional de colaboración además estos veinte proyectos se han dividido en dos fases como bien ha dicho usted

y otros diez proyectos que si bien se comenzarán a desarrollar en dos mil catorce

en consecuencia el plan kultura auzolanean se ha diseñado y se está desarrollando desde una perspectiva de factibilidad y operatividad la actividad llevada a cabo en el marco de este plan una vez designadas las personas que forman los diversos equipos ha sido muy diversa e intensa de este modo

se han formado ocho grupos de trabajo y se han celebrado nueve reuniones los grupos de trabajo se han formado entorno a ocho proyectos cuatro de ellos transversales

bueno en realidad solamente queda uno puesto que hoy mismo a las diez y media

por tanto queda pendiente de abordar la mejora de las vías para exhibición comunicación y difusión del arte vasco cuya primera reunión se celebrará el próximo cinco de noviembre

auzolanean un trabajo desarrollado desde la base del entendimiento y la participación y es por ello que tengo plena confianza de que este plan es el instrumento adecuado para canalizar las estrategias y prioridades y lograr el éxito de la gestión del ámbito cultural en euskadi